muchas gracias presidenta buenos días a todas y a todos decía el señor

que el mayor proceso de privatización que existe a día de hoy en el conjunto de españa es la ocupación por parte de los partidos políticos

esta afirmación que nosotros compartimos resume perfectamente bien cuál es la opinión de upyd

e i te be es decir nosotros somos partidarios de que el consejo de administración de e i te be no sea elegido por parte de los partidos políticos sino que se haga de otra

nosotros no vamos a participar en esta votación no estamos de acuerdo con que sean los partidos políticos los que designen a los miembros del consejo de administración de e i te be nosotros hemos sido coherentes ahí donde tenemos representación en este asunto

en este caso también en el parlamento vasco vamos a ser coherentes y efectivamente nosotros desde un primer momento renunciamos a presentar candidato para

que les digo porque pensamos que no tienen que ser los partidos políticos los que estén dentro de ese órgano

hay que hacer la elección del consejo de administración de e i te be de otro modo nosotros hemos renunciado a estar presentes en este en todos los lugares donde tenemos representación antes lo hicimos en radio televisión española y también lo hicimos en telemadrid se trata de aportar nuestro granito de arena para despolitizar estos órganos digo que decía

es la ocupación por parte de los partidos políticos de todos los espacios de la sociedad cajas de ahorros justicia o también televisiones públicas por lo tanto nosotros no estamos de acuerdo creo que lo que necesita

e i te be es un consejo de administración que defienda la pluralidad que defienda la profesionalidad que defienda la independencia que defienda la objetividad

y que defienda la veracidad en definitiva el servicio público creo que es mala idea tratar de llevar

las luchas partidistas entre los diferentes partidos políticos nosotros por lo tanto apoyamos otro sistema de elección de los miembros del consejo de administración de e i te be que sean elegidos en función de sus méritos y capacidad

a la que cualquier persona pueda concurrir tal como se hace por ejemplo en la bbc por lo tanto estas son las razones por las cuales nosotros no participaremos

de todos los espacios de la sociedad creo que sería una buena manera de despolitizar

social la vida política despolitizar en el buen sentido del término

y por eso no votaremos y no entregaremos el correspondiente papel en la urna correspondiente

empezamos por el nueve arriola lopez ignacio maría

rosa miren bederatzi boto

casado cuevas dámaso cava mesa begoña

iñaki eta

pagola petrirena rosa miren eta nulo bat

cuando elaboramos este texto nos guiaron varios principios el principal

como primer paso para tratar de evitar la pérdida de confianza de la ciudadanía hacia la gestión de lo público y sus gestores y otro principio era el de tratar de que alcanzase el máximo consenso por eso partimos de la base del proyecto

partiendo así de la base de lo propuesto por todos los grupos de esta cámara la presente proposición de ley avanza y profundiza en este camino ampliando el concepto de cargo público

el mayor universo posible de quienes ejercen este tipo de funciones públicas en el sector público de la comunidad autónoma del país vasco y regulando los principios obligaciones garantías procedimientos y sanciones que procuran la primacía del interés general la finalidad de la ley esa sí

y también de un deber social pues trata de preservar la legítima confianza que la sociedad deposita en quien gestiona el interés común así como la transparencia de su actuación

siete disposiciones adicionales res disposiciones transitorias

que abordan los aspectos necesarios para regular de una manera eficaz y transparente esta materia

estableciendo los principios generales que rigen el código de conducta de los cargos públicos la regulación de las situaciones que pueden generar conflictos de intereses

todo ello de forma que se garantice la prevalencia del interés general el ámbito de aplicación comprende el conjunto de cargos públicos al servicio del sector público de la comunidad autónoma y otros que se definen en la ley y que se entiende necesario que queden sujetos además de la inclusión del lehendakari de los miembros del gobierno y de los altos cargos de la administración contemplados ya en la ley del ochenta y uno de gobierno la ley extiende su campo de aplicación

que estando al servicio del sector público desempeñe funciones directivas o asimiladas y su nombramiento resulte independiente de los procesos de selección regidos por los principios de publicidad y concurrencia competitiva la referencia a los principios de publicidad y concurrencia como línea que marca la aplicación o no de esta ley

el cual está llamado a constituir un factor decisivo de modernización en las administraciones públicas y en cuya selección rigen los principios de mérito y capacidad al directivo público y al personal eventual les será de aplicación la normativa de la función pública

o representativas de intereses sociales económicos o culturales o funciones consultivas y de control asimismo se aplica el régimen legal a los miembros de los órganos que sus normas de creación los vinculan funcionalmente al parlamento vasco no obstante en relación con estos últimos órganos se condiciona la aplicación de esta ley a que esta resulte lógicamente compatible con su legislación

la presente ley apartándose de los antecedentes de la ley del ochenta y tres no incluye en su ámbito subjetivo a los órganos forales de los territorios históricos si bien les serán de aplicación los principios de actuación y conducta y las reglas relativas al conflicto de intereses a la dedicación exclusiva y a la retribución única contenidos en esta ley con ello lo que se trata es de respetar la autonomía foral garantizada

busca dar a la ciudadanía la garantía de que quien desarrolla funciones públicas en razón de un nombramiento o designación basado en la elección parlamentaria

fundado en atención a las capacidades que se consideren necesarias para la dirección de los asuntos públicos sin participar en procedimientos de selección competitiva

y antepone en todo caso los intereses generales a los particulares con el propósito de aportar certeza jurídica en el desarrollo y aplicación de esta ley

de un catálogo de cargos públicos que sirva de instrumento de identificación e información del elenco de cargos públicos que se encuentran sujetos al régimen jurídico

se dedica a la importante función de establecer los principios generales que informan el código de conducta de los cargos públicos se diferencian los principios de actuación de los de conducta estando los primeros más ligados a la ética del servicio y los segundos al comportamiento

es evidente que sobre todo en el primer caso los principios mencionados ya forman parte de la ética pública o de las normas propias de un estado de derecho ahora bien se entiende que en una ley de estas características es necesaria la manifestación y constancia de los mencionados principios así es necesario recordar la esencia

en un régimen democrático y por lo tanto la obligación de todo cargo público de promover y respetar esos principios básicos que componen el código de conducta

que pueden enfrentarse en el ejercicio de dicha función pública se entiende que cuando se produzcan determinados supuestos el cargo público debe abstenerse

y con la finalidad de controlar adecuadamente y de conocer esos posibles conflictos de intereses se establece la obligación de declarar las actividades realizadas

anteriores al nombramiento finalmente el capítulo recoge dos aspectos básicos del régimen del cargo público la dedicación exclusiva y la retribución

la dedicación exclusiva supone la incompatibilidad del ejercicio del cargo con cualquier otra actividad a excepción de las permitidas en la propia ley o las que el gobierno autorice expresamente por razones de interés público por su parte la retribución única

con cargo a los presupuestos públicos así como cualquier remuneración que provenga de una actividad privada salvo las excepciones establecidas

se establecen las actividades compatibles la ley sigue la mecánica de la definición concreta de las actividades que pueden ser desempeñadas siendo incompatibles todas las demás se diferencia cuatros tipos de actividades compatibles privadas públicas electivas

su ejercicio no debe limitar o comprometer el ejercicio del cargo público ni perjudicar el interés general se identifica la competencia para analizar conocer y determinar

así como en los casos necesarios conceder la necesaria autorización para su ejercicio

se regula también de forma detallada la prohibición de desempeñar determinadas actividades privadas durante los dos años siguientes al cese debiendo de ser declaradas con carácter previo a su inicio para su análisis por el órgano competente

con las empresas o sociedades privadas con las que hubieran tenido relación directa debido al desempeño de las funciones propias del cargo

aborda la obligación de declarar las actividades y los bienes y derechos patrimoniales a efecto de control y garantía de la objetividad e imparcialidad en el desarrollo de las funciones públicas de los cargos comprendidos en el ámbito de aplicación de la ley se diferencia entre la declaración de actividades y la declaración de bienes y derechos patrimoniales

el capítulo quinto se encarga de regular los órganos de gestión y control de las obligaciones establecidas en la ley

el capítulo recoge también las obligaciones de información parlamentaria por último el capítulo sexto se encarga de regular el régimen sancionador

de esta ley tipifica independientemente de otro tipo de responsabilidades

su sanción y medidas complementarias correspondientes el procedimiento y los órganos competentes para su instrucción y su resolución en las disposiciones adicionales

de los preceptos relativos al código de conducta y buen gobierno a las diputaciones forales y su sector público y a las entidades locales

especificidad recogida en sus correspondientes leyes

la comunicación por las entidades del sector público de los nombramientos que efectúen y se adapta a la normativa disciplinaria de función pública al deber de secreto que se impone a los empleados públicos al servicio de los órganos de aplicación de la ley las disposiciones transitorias finalmente establecen la obligación de renovar las declaraciones efectuadas conforme al régimen vigente con anterioridad a esta ley lógicamente cuando se apruebe y la revisión de las

con anterior a su entrada en vigor esta es en síntesis la proposición de ley que hoy el grupo socialista somete a la toma en consideración de esta cámara

presidenta efectivamente nosotros votaremos a favor de la toma en consideración de esta proposición de ley planteada por el grupo socialista lo cierto es que esta proposición de ley y el discurso planteado por la señora

en la necesidad de avanzar y profundizar en el camino abierto por la ley de gobierno del año mil novecientos ochenta y uno y la ley de incompatibilidades del año mil novecientos ochenta y tres

más transparencia menos opacidad y más independencia en el desempeño de las funciones públicas por parte de los cargos públicos a los que esta proposición de ley

control exhaustivo de los cargos públicos se ha hablado de transparencia de confianza interés general conceptos que son ciertamente muy interesantes así se plantean cuestiones que en nuestra opinión son cuestiones de gran interés que nosotros compartimos la elaboración de un código ético y de buen gobierno a fin de promover la máxima publicidad y constancia de los principios que inspirar al servidor público

de la función pública la obligación de declarar las actividades realizadas durante los dos años anteriores al nombramiento la dedicación exclusiva y la retribución

privadas durante los dos años siguientes al cese la obligación de declarar las actividades y los bienes y derechos patrimoniales o la creación de la oficina de conflictos de intereses entre otras cuestiones que ya digo que nosotros compartimos

interesantes dicho esto también debemos añadir que dentro

vía enmiendas que nosotros plantearemos y supongo que también plantearan el resto de grupos o tocando y modificando otras leyes distintas a esta consideramos hay mucho terreno donde avanzar

en lo que se refiere a la transparencia y la eficacia y eficiencia de los gestores públicos en lo que se refiere a la necesaria regeneración de la democracia en lo que se refiere a la necesidad de que los ciudadanos recuperen la confianza en la política y en los políticos y en lo que se refiere a acercar a los ciudadanos es decir esta proposición de ley es necesaria pero es insuficiente hay que promover otros cambios legales y otras medidas esta proposición de ley por lo tanto es necesaria para recuperar la confianza de los ciudadanos y ganar en transparencia pero es insuficiente es imprescindible en nuestra

otro tipo de medidas que expresaré después esquemáticamente aunque algunas de las cuales ciertamente no se circunscriban a lo que pretende abarcar esta proposición de ley pero en todo caso como aquí se ha hablado de control exhaustivo de los cargos públicos de transparencia de confianza y de interés general me parece interesante señalarlas al menos de manera esquemática para recuperar la confianza de los ciudadanos hay que ganar en transparencia y trabajar

pero también luchar sin descanso contra el amiguismo y contra la corrupción política modificando leyes injustas o que se han demostrado claramente insuficientes para luchar contra esa lacra y defender por encima de todo el interés general algunas ideas que nosotros planteamos como absolutamente indispensables

a este parlamento en las próximas semanas o en algún caso incluso ya hemos debatido sobre la materia por ejemplo impedir que encausados por corrupción política puedan ir en listas electorales o que continúen en sus cargos públicos en su caso propuesta que ustedes rechazaron hace quince días

de la cámara excepto un servidor o sancionar penalmente mediante un tipo delictivo autónomo

por parte de los partidos políticos tanto de sus estados contables como de su patrimonio social o establecer un delito específico para perseguir la financiación ilegal de los partidos políticos aplicable tanto a la financiación ordinario a la electoral o incorporar a nuestra legislación penal el denominado delito de enriquecimiento ilícito o injusto de los cargos públicos electivos propuestas que ya están registradas en esta cámara y que se debatirán próximamente o reforzar un tema ciertamente interesante

sancionando a los gestores públicos que hayan causado daños patrimoniales a los bienes o al caudal público se pueden hacer otras

por ejemplo la eliminación o limitación de determinadas

o nuestros ex consejeros algunas de las cuales siguen a día de hoy vigentes además podríamos hablar de la necesidad de que los partidos políticos

tanto los generales como los electorales y que publicitaran los gastos de sus mítines de fin de campaña entre otras medidas de mucho interés para el conjunto

esta proposición de ley es absolutamente necesaria pero no es suficiente para recuperar la confianza de los ciudadanos y ganar en transparencia y por eso he introducido la necesidad de impulsar y aprobar otras iniciativas expresadas de manera esquemática aunque

a lo que pretende abarcar esta proposición de ley pero que me parece interesante traerlas hoy aquí porque

control exhaustivo de los cargos públicos transparencia confianza de los ciudadanos e interés general y me parecen absolutamente indispensables y se debatirán en esta cámara en las próximas semanas medidas

que se deben implementar para ensanchar la democracia y ganar en transparencia

gracias señora presidenta señorías intervengo en nombre del grupo popular para

socialista consideramos que el acceso a la información pública y las normas de buen gobierno deben ser los ejes fundamentales de toda acción pública

se recogen en la iniciativa que contienen obligaciones concretas de publicidad activa para determinados cargos así por ejemplo materia de contratos subvenciones presupuestos o actividades de altos cargos existe

sin embargo esta regulación resulta insuficiente en la actualidad y es evidente que no satisface las exigencias sociales del momento

y que se eleve a rango de ley principios éticos y de actuación que deben regir la labor de los miembros del gobierno y asimilados como son los de eficacia austeridad

de ley tiempo tendremos para ello pero sí quisiera manifestar que desde el grupo popular

como todo lo referente a la transparencia y al derecho de acceso a la información por parte de los ciudadanos así como el capítulo que recoge el régimen sancionador evidentemente aquellos aspectos que consideramos o echamos en falta en este texto que se nos ha presentado

enmiendas por tanto señorías no es mi intención alargarme en esta intervención tiempo tendremos en la ponencia para poder

de diferentes enmiendas que se presenten pero sí que antes de finalizar sí me gustaría hacer una consideración creo que debo hacerla

la señora mendía tuviera un texto tan avanzado en una materia que según sus propias palabras era crucial

durante su mandato hasta hace pocos meses y

es una forma de buen gobierno esto de salir del gobierno con proyectos de ley debajo del brazo y traerlos aquí y presentarlos como proposiciones de ley de parte porque creo que probablemente

dedicó mucho tiempo y sus altos cargos dedicaron mucho tiempo a la elaboración de este proyecto de ley pero seguramente también participaron en el mismo funcionarios que están al servicio del gobierno vasco y por aquello de que estamos tratando de normas de buen gobierno nos parece que como no es la primera vez y ha sido reiterado la postura del grupo socialista en esta legislatura

a mí me parece que hubiera sido más razonable pero bueno esto ya entra dentro de cada uno

que un proyecto de ley en el que ha estado trabajando un gobierno pues se deje a que el siguiente gobierno el siguiente consejero de turno

ese trabajo ya realizado y lo digo porque no es la primera vez que nos encontramos con ese proyecto de ley que el partido socialista se ha traído debajo del brazo y lo presenta

dagoena baino y a veces son temas que son difíciles de normalizar difíciles de meter en una normativa en un articulado pero que realmente pienso que son los puntos que tendrían que tener en mente

los cargos públicos honradez corrección lealtad eficiencia transparencia austeridad y vocación de servicio siete puntos que

en la campaña electoral en octubre un compromiso ético que a veces es difícilmente encajable en una normativa

otros conceptos difícilmente encajables en una normativa

que deberían contemplarse como por ejemplo el esfuerzo por fomentar la participación ciudadana el respeto al oponente político

y la asunción del compromiso de que el diálogo sea el instrumento de la actividad política como digo conceptos todos ellos difícilmente encajables en una normativa pero que considero fundamentales

de la actividad política y sobre todo de la actividad de los cargos públicos eta amaitzeko kontsiderazio bat nire ustez ere garrantzitsua eta zera da

la ciudadanía demanda y exige transparencia y la eliminación de toda opacidad que propicie que se pueda dar cualquier tipo de chanchulleo y la ciudadanía quiere saber y tiene derecho a saber a qué se destina su dinero

en este sentido ya anunció el señor consejero erkoreka la intención de incluir en el calendario legislativo la ley de la administración pública vasca anunció también un compromiso de desarrollar una política de opacidad cero y como el movimiento se demuestra andando por de pronto

inferior a un mes mientras que en el parlamento se tramita esta proposición de ley el gobierno elaborará un nuevo código de ética y buen gobierno

todos los altos cargos y el personal de confianza del gobierno y además por lo que adelantó también el señor consejero se subirá el listón

a las exigencias y demandas de la ciudadanía y es que a diferencia del código de buena conducta aprobada por el gobierno del lehendakari lópez

mecanismos de seguimiento y evaluación porque como digo el anterior código no disponía de ningún mecanismo de control nada de nada y con la que está cayendo pues no se entiende y señora mendía se lo tengo que decir

que han transcurrido escasamente dos meses desde que el señor urkullu es lehendakari y otra vez

ese calendario que ustedes tardaron siete meses en traer a este parlamento no han transcurrido ni los cien días de gracia y otra vez les entran las prisas ahora se convierte en prioridad antes no lo era pero bueno para su tranquilidad

en menos de un mes tendremos un código ético con mecanismos de control superando su versión

porque no entiendo y hoy usted la verdad es que en su primera intervención

cómo usted no impulsó y aprobó esta ley cuando tenía responsabilidades de gobierno es más este proyecto estaba en su calendario legislativo

en la previsión inicial se fijaba su aprobación para el segundo trimestre del dos mil once se modificó esta previsión en el consejo de gobierno de seis de julio de dos mil once pasando al segundo semestre del dos mil doce todos sabemos que ni tan siquiera llegó a aprobar

y que no remitió nada a este parlamento y la cosa entendemos aún si cabe menos si además tenemos en cuenta que este texto guarda notables semejanzas con el que quedó pendiente de la legislatura usted misma en la comisión reconoció que rescataron el texto y que hicieron las modificaciones que estimaron oportunas

añadía en la comparecencia que no quería echar por la borda los recursos económicos

en la elaboración del mismo y quiero que caiga en cuenta señora mendía que esta manifestación supone un reconocimiento expreso de que su grupo parlamentario ha presentado como proposición de ley un texto que ha sido elaborado con cargo a los recursos de gobierno y por lo tanto el hecho

algo que ha sido sufragado con cargo a los impuestos de todos los ciudadanos y ciudadanas vascas no considera la señora mendía que se está obteniendo un beneficio para su propio partido

y que dicho coste ha sido sufragado con cargo a los recursos públicos no le parece a la señora mendia que vulnera su propio código ético
le recuerdo lo que dice el bostgarrena artículo del otadui andrea amaitzen joan mesedez

bukatzen dut tendremos ocasión de ir trabajando en la ley e ir presentando nuestras enmiendas pero adelanto que nuestro grupo está valorando la posibilidad de hacer extensiva la ley a los cargos que han abandonado el gobierno en la anterior legislatura

borrar ante la ciudadanía cualquier sombra de duda

de librarse de los controles a los que ahora considera que hay que someter al gobierno

espero señora presidenta que tenga la misma generosidad con todos los grupos de esta cámara que ha tenido con la portavoz del grupo nacionalistas vascos mendia andrea parkatu hogeita hamar minutu ziren

hasiko naiz orduan creo que hay unos puntos

porque voy a empezar por lo que nos une y luego puedo terminar por donde lo que parece que discrepamos o que bueno algunas

compartimos la necesidad de hacer una ley de transparencia no de trabajar por la opacidad cero que evidentemente

lo cual nos ha hecho cosechar numerosos premios que este gobierno ahora puede recoger por lo tanto es necesario elaborar una ley de transparencia lo que hoy hemos traído a la toma de consideración de esta cámara es

es algo que tiene un carácter interno de gobierno que evidentemente es una garantía para los ciudadanos pero evidentemente es algo interno de gobierno es decir aquellos que ocupan

en el sentido más extensivo que se ha podido definir posible y más flexible para que aunque existan cambios en el gobierno no tengamos una lista cerrada

por lo tanto esto es una ley que de lo que trata es de dotar de instrumentos a la administración para que la ciudadanía pueda tener una garantía y una confianza a sus cargos públicos porque sabe que se controla lo que hicieron antes de llegar al cargo lo que hicieron durante el tiempo que estuvieron en el cargo y lo que están haciendo al abandonar el cargo por lo tanto eso es

con esta ley por lo tanto yo no seré partidaria desde luego de mezclar una ley de transparencia aunque comparto desde luego lo que ha dicho el

pero no me parece que técnicamente legislativamente es oportuno mezclar las dos cuestiones porque yo creo que son ámbitos

diferentes yo creo que lo vemos todos yo creo que es necesario traer esta ley lo que yo no entiendo

porque ahora estemos en la oposición y antes estuvimos en responsabilidades de gobierno es que acaso no tenemos derecho a una iniciativa legislativa a una iniciativa política es eso lo que usted insinuá que los socialistas vascos debemos permanecer callados porque hemos estado en el gobierno que por eso debemos perder las iniciativas políticas en este país

de verdad su argumentación yo creo que

no pudimos traerlo a la cámara pero creo que es una ley que además reconozco que así como hay otras portavoces que les encanta buscar la discordia a mí por naturaleza me gusta buscar la concordia y trato de buscar el acuerdo con todos los grupos de la cámara

que en la legislatura donde se hizo esta primera ley que yo rescaté para tratarla de texto base porque tenía además las enmiendas de todos los grupos de la cámara fue causada

director a la sazón que tenía una cierta incompatibilidad

creo señora que es necesaria esta ley y que ustedes perfectamente también lo podían haber presentado a inicio de la legislatura debo decirle además que este grupo parlamentario por lo menos los años que yo llevo y me consta que siempre ha sido así cuando hemos presentado

los parlamentarios así que si usted quiere hablar e utilización de recursos públicos diga que evidentemente yo cobro un salario público porque soy parlamentaria pero lo he hecho

se aprobó en esta cámara por mayoría y ustedes fueron incapaces de poner en marcha tuvo que venir mi gobierno

evidentemente luego hubo enmiendas y el texto se mejoró porque para eso está esta cámara para eso están los servicios letrados de esta cámara para mejorar los textos por lo tanto yo creo que primero tenemos derecho a la iniciativa política creo que

esta ley la traemos porque creemos que es oportuno y necesario

esperamos que el gobierno en su calendario legislativo incluya una ley de transparencia sino tranquilos que nosotros traeremos aquí una ley de transparencia y por otro lado también señora otadui

llevan ustedes casi cien días en el gobierno y no hemos visto todavía ninguna iniciativa más allá de ceses y nombramientos por lo tanto

a traer esta ley al parlamento espero que el código ético ese que ustedes están mejorando tanto

que es de cumplimiento con el ordenamiento constitucional del estado democrático

del código ético vigente actualmente en el gobierno que por cierto no lo han derogado nada más y muchas gracias

upyd taldearen ordezkaria den maneiro jaunak dauka hitza entro de manera muy breve para decir que

y el resto de grupo presentaremos las enmiendas correspondientes para que efectivamente pueda mejorarse

legales qué otro tipo de iniciativas podrían plantearse para garantizar que haya más transparencia

se debatirán en esta cámara espero el apoyo del resto de grupos

indispensable aprobar una ley de transparencia una ley de transparencia autonómica pero también una ley de transparencia nacional durante

que no tenía una ley de transparencia

negando durante largos años a poner en marcha esa indispensable ley de transparencia posteriormente se presentó una ley de transparencia en la que no se incluía a sindicatos organizaciones empresariales partidos políticos e incluso la casa real nosotros hemos venido insistiendo en la necesidad de que existía a nivel nacional una ley de transparencia

sindicatos organizaciones empresariales y casa real lo cierto es que durante décadas tanto el partido popular como el partido socialista se han venido negando a ello

cuanto antes nada más y muchas gracias eskerrik asko maneiro jauna

se queda sin nada dos cosas la primera yo no le quiero quitar ninguna iniciativa señora mendia está en su perfecto derecho

yo lo que creo es que no está bien que con los recursos públicos que se ha dedicado a la elaboración de un proyecto de ley

el partido socialista como le he dicho se los lleve debajo del brazo y los traiga aquí

y lo presente como una proposición de ley sin más pero creo que debía quedar constancia porque me parece que es algo que lo estamos viendo en varias ocasiones y creo que además usted no lo ha escondido con lo cual era simplemente dejar constancia de esto tiempo tendremos para poder debatir sobre el contenido a nosotros nos parece que el tema del acceso a la información y la transparencia también podría tener cabida en este proyecto sobre todo porque si no nos vamos a encontrar con que vamos a tener leyes diferentes regulando un aspecto que a nosotros nos parece que podría regularse en su conjunto

a la normativa y no tengan que estar buscando determinadas cosas por diferentes leyes y luego otra cosa al señor maneiro estamos en el parlamento vasco yo me alegro que usted haya sacado que ha sido iniciativa del gobierno de mariano rajoy y que se va a debatir en el congreso de los diputados como es la ley de transparencia con todas las modificaciones además del último acuerdo al que se ha llegado

pero quiero recordarle que estamos en el país vasco no vamos a debatir sobre ese proyecto de ley porque no nos toca pero sí vamos a tener la oportunidad de en el ejercicio de nuestras competencias poder tener una legislación que afecte al gobierno vasco a sus altos cargos y que mejore la transparencia por tanto

este proyecto y esperemos que cuanto antes vea la luz

geratu da horregatik gorrian ipini da hechos son amores y no buenas razones

sartzen zizulako bestela hori ere ez en la primera intervención

manifestado que estamos totalmente de acuerdo con esta iniciativa cómo no lo vamos a estar además

vamos a trabajar presentando nuestras enmiendas para que se mejore el texto lo que no vemos adecuado es que usted

de un trabajo que había realizado el gobierno como también otros portavoces le han recordado veo que está también intrigada en relación con el código

que este código lleva aparejado controles y que se podrá hacer un seguimiento cosa que vuelvo a recordarle

y de manera muy breve porque hemos alcanzado un acuerdo entre varios grupos de la cámara para posibilitar la aprobación de un texto

ya hemos debatido en esta cámara en varias ocasiones en comisión y en pleno

un asunto en el que aralar y también el partido nacionalista vasco trajeron aquí reclamando un estudio al gobierno

un modelo distinto de gestión de los comedores un modelo autónomo y específico para cada centro es verdad que en aquel caso

trajeron una propuesta similar en el año dos mil diez decían que los comedores escolares no satisfacían en aquel momento las necesidades

ni tampoco de los centros hoy en su propuesta bildu ya dice que no se satisface

de usuarios parece que en estos dos años algo se ha hecho y desde luego han entendido

con una gestión directa de los comedores escolares porque en todo caso han cambiado de no satisfacer a nadie

a un sector a un cierto número de usuarios según dicen en la justificación de su propuesta se plantea una gestión individualizada y se trata de contraponer esta a la gestión directa bueno yo creo que se ha puesto en marcha una acción directa para universalizar el servicio

un modelo que está funcionando que efectivamente puede mejorarse y nosotros creemos que se puede mejorar y que seguramente el departamento

hacer una evaluación concreta para ver de qué manera podemos mejorar las condiciones y la prestación de ese servicio nosotros

en concreto continuar con ese tratamiento en relación con los comedores escolares y tratar de implementar mejorar y ampliar las ayudas y las becas

para aquellas familias que están sufriendo especialmente en este momento la crisis económica también a realizar una evaluación del estado actual de esa gestión de comedores para seguir avanzando y tratar de mejorar en lo que sea posible de ese servicio es verdad que en el dos mil diez se aprobó en esta cámara

una propuesta que instaba al gobierno a presentar en un plazo concreto

sobre la gestión de los comedores escolares se le volvió a reclamar al gobierno en dos mil once

a este parlamento un estudio sobre esa

que a día de hoy dos mil trece el gobierno socialista no trajo ningún estudio en relación con esta materia nosotros seguimos pensando que sería oportuno y por eso hemos tratado de incorporar a la enmienda de transacción que el departamento actual de educación realice esa evaluación que conozcamos exactamente cuáles son las fortalezas y debilidades de ese sistema de gestión que podamos conocer exactamente

los problemas y las reclamaciones de determinadas familias y desde luego cuál es la situación actual porque no se le puede dar a esto la vuelta

estamos hablando de que la mayoría de los ochocientos y pico centros de nuestra comunidad tienen en este momento establecido un sistema de gestión directa y que muy pocos centros tienen

suficiente para afrontar una gestión directa de los comedores escolares

de los centros están cómodos y defienden el planteamiento actual de gestión directa y desde luego ustedes saben

proposición no de ley que desde luego la inmensa mayoría de los centros de nuestra comunidad en este caso no podrían gestionar de manera autónoma ese servicio porque ni si quieran tienen espacio para hacerlo ni tienen las infraestructuras suficientes ni la cocina ni en este momento muy difícil la financiación para acometer las inversiones por eso yo creo que es mejor y yo creo que es más positivo y más práctico que el departamento nos presente cuanto antes una evaluación

de qué manera y desde esta perspectiva se puede mejorar la prestación del servicio desde luego que nosotros estamos de acuerdo en que

todos los elementos que tienen que ver con la seguridad alimentaria y que en este caso esos conceptos y esos aspectos que incorporamos a la enmienda de transacción que tiene que ver con la variedad de los alimentos en los menús la utilización

de los alimentos también de la manera razonable y teniendo en cuenta también el uso racional de los recursos públicos se atienda a las recomendaciones de los productos de nuestro en torno etcétera y desde luego

de hábitos saludables entre los alumnos pero yo creo que eso es algo que se viene haciendo y lo que tenemos que hacer ahora es tratar de ver cómo mejoramos

las cifras en las que nos estamos moviendo nos estamos moviendo en más de ochocientos centros educativos

alumnos comiendo a diario es el mayor comedor de euskadi sin duda alguna

comensales y con un gasto un coste público para las arcas públicas de noventa millónes de euros treinta millónes de euros que aportan directamente las familias usuarias más les diré durante nuestro tiempo

logramos consolidar un cuarenta y cinco por ciento de usuarios

precisamente por sufrir situaciones de paro familiar por tanto estamos trabajando en una economía a gran escala no es una cuestión de pronto de

de poder llevar ese comedor los comedores hoy atienden a seiscientos y setecientos alumnos no es una cuestión

tremendamente seria llevamos más de quince años en los que no ha habido ni una sola intoxicación alimentaria y las exigencias a las empresas de catering son altísimas y estamos efectivamente

una economía de costes a escala donde lo que se exige en los pliegos de cláusulas a las empresas es desde la cadena de conservación cuidado servicio formación es altísima solo

pueden entrar a esto pero efectivamente yo también me he sorprendido favorablemente en este caso de que el partido nacionalista vasco haya cambiado afortunadamente su posición se ve que no es lo mismo predicar que dar trigo no es lo mismo y

una cura de realismo al entrar al gobierno porque en el dos mil diez y más en el dos mil once precisamente cuando estábamos

una huelga del veinte por ciento de comedores de euskadi solo el veinte por ciento de comedores de euskadi pero que estaban trastornando profundamente la vida de las familias

y los agentes del sector nos vienen reclamando aquí

nos vienen reclamando aquí un cambio de modelo miren señorías

muchos desafíos muchas cuestiones a las que atender muchísimas cuestiones y nos están amenazando ayer precisamente con unos recortes con unos descensos de lo que significa el presupuesto público

que afectan también a la investigación que afectan también a la sanidad tremendamente serios y desde luego no es momento para cambios

un tema de experimentación como reclama la señora ubera y le voy a decir por qué porque ya hay ocho o nueve centros que están

el régimen que tenían previamente y no se han cambiado pero el resto

hecha por mi predecesor en el año dos mil hecha por el señor

el movimiento que ha habido con esa normativa ha sido justo el contrario es decir pasar de la gestión de los comedores

porque es la administración educativa la que es responsable directamente

nuestro desafío es uno

de calidad ciertamente para seguir con los procesos de mejora continua para seguir naturalmente tratando y exigiendo a las empresas de catering como venimos haciéndolo que utilicen material de primera calidad que hagan un servicio profesionalizado

con los alumnos en su tiempo pero hay otro

importantísimo ese es el desafío en esta materia

la administración pública esté completamente atenta a las nuevas necesidades de ayudas y becas de comedor que se están produciendo

este es nuestro desafío porque mire señora ubera no se puede en este momento atender a todos los asuntos a la vez las cocinas y más cocinas es un coste

entrar en ineficiencias y en duplicidades mientras que

y ayudas a comedor ahí es donde verdaderamente tenemos que hacer nuestros esfuerzos económicos y financieros

para mayor igualdad y sabe por qué porque tenemos estricta observancia al principio de igualdad nosotros hemos dicho no

porque nuestros niños y niñas no queremos que se dividan

yendo a comer aquellos que tienen recursos y yendo con su tupper aquellos que no los tienen el tupper en sí no tiene la culpa

en una criatura de corta edad sí nos parece importante por tanto el desafío es económico el desafío es

un desafío de equidad y naturalmente de continuar con la calidad en el servicio que es y que tenemos altamente profesionalizado y que funciona